señora presidenta para decir que no somos partidarios de la enmienda de eh bildu

de las cajas que ya sabíamos que se opusieron a la creación del banco que ya sabemos que se opusieron a las fundaciones bancarias pero todo eso fue hace ya mucho tiempo y hoy estamos en una contradicción suya porque a pesar de arrogarse

en fin este parlamento con una minoría socio política pero con sus votos en contra aprobó todas las leyes anteriores

entonces yo eso no se lo voy a discutir sí le digo su contradicción echa en cara al gobierno vasco que es que renuncia asumir

y como no lo ha hecho y como no lo hizo está vigente la ley del estado perdón la del dos mil trece

a que aquí se apruebe una que rija las competencias que esta cámara decida que tenemos y por eso simplemente pues evidentemente nosotros votaremos en contra

no estamos ante una ley más ni ante una ley menor estamos ante un proyecto de ley que después de las instituciones públicas después de

una ley que va a un sector institucional que complementa y que sigue en importancia a la función social a la política social que en este país se hace por lo tanto me parece bien que suscitemos todos los debates a este respecto y que tratemos de ser minuciosos en el ámbito de nuestras competencias

la mejor ley que complemente a esa ley de bases del estado y que cumpla con estas funciones de desarrollo normativo

a través del estatuto de autonomía el señor isasi en su enmienda de totalidad plantea justifica políticamente esa enmienda diciendo que estamos en un escenario de

de este modelo del sistema financiero y cada vez hay

debilidad en el papel social y yo creo que ese es un diagnóstico razonable

compartido también por nosotros aunque eso lo lleva a un desenlace que es

y usted lo sabe su enmienda de totalidad es una enmienda que permite a su grupo hacer testimonio político pero que sabe que no tiene ninguna viabilidad porque no hay en el estatuto de autonomía competencias

para desarrollar este sistema financiero económico y social que tiene en esos aspectos capacidad de regulación

aunque sí luego hay preservado una capacidad de desarrollo por lo tanto el desenlace de lo que plantea la enmienda de totalidad

exagerada es imposible no guarda proporción con el análisis que hace de lo que puede suponer esta ley y por eso ya que usted nos pide el apoyo

que retire la enmienda de totalidad y que se fije en los márgenes donde sí podemos hacer política porque ciertamente este proyecto de ley que nace de la ley básica del estado y que nace de las recomendaciones europeas es un proyecto que ni es definitivo o es una ley

que ni es definitivo ni es irreversible de hecho no hace muchos meses en febrero del año pasado el comité económico y social europeo un importante informe después de la experiencia de la crisis y después de la experiencia de todas las modificaciones que ha habido políticas y legislativas sobre el sistema financiero diciendo que en la biodiversidad del sistema financiero europeo las cajas y las cooperativa de ahorro

imprescindibles seguían siendo necesarias por su proximidad seguían siendo necesarias por su función social y por lo tanto recomendaba su mantenimiento

como también usted ha reflejado con algún dato en alemania en francia en otros países en españa mismo el papel

este segmento de la actividad financiera económico y social

de la capacidad económica y en algunos casos como en el caso de francia y alemania incluso lo supera es decir ni las cajas ni las fundaciones en esa modalidad diferente pero con un mismo sentido están

ni son inviables ni se justifica su desaparición en base a los excesos que ha podido haber a los abusos y a los errores que ha podido haber y se han podido cometer a lo largo del tiempo es evidente que en esta

en esta coyuntura de crisis económica se aprovechó esta circunstancia fundamentalmente por el poder económico y político del sistema bancario para tratar de cargarse lo que esto significa y para tratar de lo que en modo de dividendos hacia la política social fuera hacia el reparto del negocio y es cierto que las cajas han sido siempre un caramelo

que todo el mundo ha querido echar mano de él porque esa capacidad de generar riqueza esa capacidad de generar beneficio

para derivarlo a la simple capacidad de obtener beneficios en este caso beneficios privados por lo tanto

en situaciones como la que le acabo de señalar en la que como decía el comité económico y social europeo por ciento cincuenta y tres votos a favor solo dos en contra y diez abstenciones hizo una rotunda del sistema de cajas y de cooperativas de crédito yo creo que estamos ante una expectativa política aquí en españa y en europa que efectivamente puede ser cambiable y que nosotros debemos de tratar de que sea cambiable qué es lo que tenemos que hacer

y en el plano de las enmiendas para que esta ley sea mejorable yo puedo compartir también con usted y de hecho me ha dado la impresión de que el consejero

muy de oficio con una cierta desgana porque es cierto que en este proyecto de ley

y prácticamente se ha limitado a hacer

ha tratado de hacer una fotocopia de lo que significa el planteamiento de las bases de la ley del estado

a el plano del protectorado

la figura es el gobierno y los organismos del gobierno las incompatibilidades y poco más es cierto que yo he visto poca ambición en este proyecto de ley por parte del gobierno vasco un gobierno que cualquier día nos sale

y otras veces cuando tiene que desarrollar instrumentos que están en el campo

resulta que se queda frenado y en este caso yo creo que hay un evidente

le invito al señor isasi ya que usted provoca este debate invito a todos los demás miembros de esta cámara a que veamos qué márgenes tenemos en este proyecto de ley a través de las enmiendas para poder

de hecho a mi me ha sorprendido mucho sus enmiendas parciales porque han hecho muchas enmiendas a las cajas

y sin embargo a las fundaciones bancarias que realmente son las que van a coger el testigo y las que comparten en este otro modelo

con kutxabank el sistema de cajas y el sistema financiero ha hecho

ha ido también muy tímidamente en ese plano de las enmiendas pero bueno pero yo creo que con el conjunto de las que se han presentado por todos los grupos podremos saberlo nosotros hemos planteado

en la participación de los territorios hemos ido hemos planteado

lo público tenga el control del banco que las fundaciones sigan siendo públicas y sigan siendo las que tienen el control del banco

que el patronato tenga una mayor presencia de lo público hemos planteado que la

este mejor definida este planificada sea más transparente hemos planteado que haya un control y una corrección en la medida que sea necesario de los planes estratégicos tanto

hemos planteado que haya planes estratégicos también en las fundaciones en fin yo creo que hay

en el que se puede avanzar bastante en el que se pueden desarrollar cosas no hay mucha normativa de referencia al respecto hay pocas leyes sobre fundaciones bancarias en españa después de la ley del año dos mil trece pero bueno algunas han ido más lejos de lo que va también este proyecto de ley por lo tanto yo creo que tenemos

políticamente a través de las enmiendas y yo lo que le planteo es que nos fijemos en eso lo que le pido a este gobierno con su influencia política

y lo que pido al conjunto de los grupos políticos es que esta necesidad de tener

y con la ley de bases la nueva situación que se crea y como digo ni es definitiva ni es irreversible y habrá tiempo

se están replanteando muchas cosas mientras tanto en este tiempo seamos capaces de desarrollarla en fin con una mayor agresividad o con una mayor posición de política vasca de autogobierno en relación con este segmento en definitiva de lo que se trata es de que las fundaciones bancarias sigan siendo las propietarias

sigan siendo las que con planes estratégicos obtengan desde los dividendos del banco la capacidad de gasto social para la obra social y que todo esto tenga el mayor contenido social la mayor función social y la mayor transparencia y esto se puede enmendar se puede modificar

y esperamos que esto se pueda resolver en el siguiente tramite

damborenea jauna zurea da hitza sí muchas gracias señora presidenta
yo evidentemente no tengo las dotes de pitoniso del señor isasi

la legislatura que viene ni cuándo empezará la legislatura que viene pero sí le puedo asegurar y creo que no me voy a equivocar que la ley básica va a seguir siendo la misma entre otras cosas porque se aprobó con un consenso más que suficiente y que nadie plantea modificarla

seguirán habiendo fundaciones bancarias y esperaremos que siga habiendo fundaciones bancarias

que en la legislatura que viene tampoco habrá cajas de ahorros aquí eskerrik asko danborenea jauna

sí presidenta señorías el señor isasi terminaba su intervención pidiéndonos el apoyo a la enmienda de totalidad después de haber hecho un agrio debate

cuando en realidad están planteando exactamente lo mismo el gobierno un proyecto de ley que es calca y copia de la ley básica

que tumbemos el proyecto de ley con lo cual nos quedamos con la ley básica porque esa regulación sigue siendo la que operaria para kutxanbank y para las fundaciones bancarias por lo tanto

este es un planteamiento absurdo es cierto que es conmovedor

diciendo no cabe más es que no tenemos más competencias cuando en cualquier momento nos sueltan desde su grupo desde su partido un discurso como desde el suyo

bueno la realidad es que funcionamos en un sistema que está organizado competencialmente y obviamente tenemos una limitación y yo lo que es planteo es que

vayamos más lejos por ejemplo yo he hablado de la composición del patronato el patronato se puede hacer con más presencia pública de la que plantea el proyecto con más presencia pública y ese es un objetivo por lo menos nuestro que somos los únicos que lo hemos planteando en las enmiendas por ejemplo

la retribuciones económicas de kutxabank

de kutxabank y de las fundaciones bancarias hoy que se persiguen otras cosas menores resulta que esto está pasando

ante las retribuciones de kutxabank y que hablemos de una equiparación con los sueldos públicos por ejemplo

que una función social propia de kutxabank y de las fundaciones que es mediante sus planes estratégicos

que esa actividad económica financiera produce en el país se mantenga cuando se está reduciendo por cierto a veces con colaboración de los sindicatos bueno podemos

que en los planes estratégicos haya obligaciones de mantenimiento del empleo nosotros hemos presentado esa enmienda podemos o no podemos hacer una planificación de la obra social de tal manera que no quede al albur de cada cual los criterios de obra social sean unos criterios consensuados sean unas políticas públicas y sostenidas tengan unos destinatarios claros y una complementación de la políticas social que se hace en este país

ustedes discuten si calcamos mejor o peor

y ustedes si somos lo que somos los vascos resulta que esta ley puede aprobarse

si fuera por unos y por otros sin ningún ejercicio de autogobierno

sin ningún desarrollo competencial y sin ninguna ambición económica y social los socialistas las tenemos y las hemos planteado

gorospe andrea zurea da hitza voy a tener que retirar eso de que el discurso del señor isasi era demagogia porque
prieto claro al lado del suyo pues es que ya no me parece tan demagógico

claro escuchándole a usted pues no me parece demagogia demagogia lo suyo señor prieto hombre o sea ha sido un ejemplo claro

juntos y juntas de la mano somos capaces y vamos a ser capaces de todo claro que sí lo que pasa es que en esta bancada usted tiene a vascos y vascas que ideológicamente desde una perspectiva de ideología política hemos crecido

se sube dando vueltas porque lo contrario nos lleva a perdernos o a morir en el camino reventados sin llegar a la cumbre que es nuestro objetivo y que es a donde vamos a llegar

y todos ustedes también vendrán con nosotros pero nosotros dando vueltas al monte hasta llegar a la cumbre respetando la normativa vigente

sin ficciones sin situarnos fuera de la realidad

y extraños intentaré ser breve dado que además entendemos que hay un amplio consenso en relación

que incluso puede llegar a ser unánime

eskerrik asko presidente andrea dado que el tercero plan

culminado su vigencia era un plan para entre dos mil once dos mil quince creemos que es importante que se conozca la evaluación

para conocer el grado de ejecución de este plan y sobre todo para conocer cuales tienen que ser los ejes objetivos y medidas del nuevo plan el gobierno vasco nos respondió respondió el consejero de empleo y asuntos sociales el señor toña

pensando en una estrategia la estrategia vasca de inversión en familia en infancia y que no era un plan que era un plan estratégico de apoyo a las familias porque se quería abordar de una forma importante la problemática de las

ese plan también ha sido sacado un poco de la manga a raíz también del propio escenario preelectoral que también parece que estamos viviendo en euskadi pero nos decía el señor consejero que ese plan era más ambicioso que un plan de familia que era una estrategia a largo plazo porque era

con unas características de ser un plan plurianual interdepartamental e interinstitucional

un borrador que se estaba manejando a parte el consejero también hizo referencia a unas jornadas de paternidad

que se iba mejor dicho porque esta interpelación se sustanció un viernes ese fin de semana en vitoria y que el gobierno vasco iba a desembolsar

doscientos millónes de euros anuales cada año pero que previamente entre el dos mil dieciséis y el dos mil veinte se iba

nosotros este anuncio desde luego lo volvemos a encuadrar en un anuncio absolutamente electoralista dentro de la propaganda escenografía de un gobierno que como

ofrece un balance de gestión bastante pobre ahora en este momento

proyectos de ley aprobados de los veintinueve que en su día se comprometió a aprobar el señor lehendakari creemos que también en materia de

en materia de impulso a la natalidad en una comunidad donde esto representa un problema estructural importante hay carencias importantes

y este grupo ha impulsado iniciativas concretas en esta cámara para que esto fuera una prioridad absoluta de este gobierno porque no vale luego hacer un acto electoralista anunciar un porrón de millónes a partir del dos mil veinte

no ver que en los presupuestos del dos mil dieciséis se haya ninguna cantidad adicional de esas cantidades como vemos en otros años han sido absolutamente insuficientes para satisfacer las necesidades de las familias vascas

ambicioso pero como digo no va acompañado de ninguna cantidad adicional en los presupuestos recientemente aprobados y además conocemos el dato que es lo que ha motivado la presentación de esta moción que falta la evaluación del tercero plan interinstitucional de apoyo a las familias

desde el grupo popular y así lo hemos puesto también de manifiesto en numerosas

como son el alargamiento del periodo de formación de los jóvenes la tardía emancipación

la brecha salarial existente en la comunidad autónoma del país vasco y también en otros sitios pero aquí concretamente las dificultades para la conciliación

no solo del resto de españa sino de europa las familias también que están en situación de especial vulnerabilidad o familias que tienen menos recursos

medidas de apoyo a las familias prestación de servicios vivienda educación sanidad conciliación el envejecimiento de la población también con unas tasas de envejecimiento de la población muy altas todo el tema de dependientes y el fomento de la natalidad

la importancia de la institución de la familia que es una de las instituciones mejor

unidad básica de articulación social agente de integración y bienestar social económico y político medio natural para desarrollar el bienestar de todos sus miembros y que constituye el principal agente de socialización y cuidado y protección

miembros por lo tanto creo que todos coincidimos

como marcos de actuación básica de los poderes públicos en las políticas de familia creo que también es importante tener en cuenta

en esta legislatura ya sé que al gobierno vasco le cuesta mirar y al partido nacionalista vasco a madrid pero creo que se ha hecho un buen trabajo

alonso en madrid en aprobar un plan que sería un buen espejo en el que mirarse de cara a aprobar el futuro plan de familia de la comunidad autónoma del país vasco

acabando y creo que me ajusto a las expectativas de mi intervención por parte de los

que las políticas en materia de familia han sido un tanto insuficientes por parte de este

volvemos a poner deberes a este gobierno en esta materia así hemos llegado a un acuerdo de transacción que recoge lo fundamental o la petición principal porque era la petición con mayúsculas que hacía este grupo de que el gobierno vasco

también de paso le pedimos al gobierno que haga una reflexión y una evaluación

el conjunto de políticas de apoyo y ayudas destinadas a las familias

impulsan en el ámbito europeo que también es uno de los espejos en los que se mira este

muy concretos que también se recogen en la ley de apoyo a las familias

políticas por lo tanto creo que es un buen acuerdo tengo que agradecer a los dos grupos

que apoya al gobierno al partido socialista y espero que como es un mínimo común en el que podemos estar de acuerdo todos los grupos

acuerdo tenga también la adhesión del resto de los grupos de eh bildu

tema del orden del día pero no por eso es el menos interesante desde luego para nuestro grupo este debate es bastante interesante y quiero empezar diciendo que existe

análisis y propuestas y este informe es de julio del dos mil catorce y este entró en nuestro parlamento es un manual bastante didáctico y creo que aquí dice todo lo que tenemos que saber y para saber

sabemos perfectamente lo socialistas de lo que estamos hablando por eso llevamos preguntándole al gobierno vasco durante toda la legislatura sobre la estrategia vasca de apoyo a las familias

que son unas cuantas concluimos que este gobierno ha pasado de puntillas ante la necesidad de afrontar un problema estructural en la pirámide de población vasca que presenta un envejecimiento de población unido a una baja tasa de natalidad y que evidencia la necesidad de poner en marcha nuevas políticas públicas de apoyo a las familias y del fomento de la natalidad

desde el gobierno vasco en octubre del dos mil catorce ya se nos indicaba que en la reunión del consejo vasco de familia celebrado el diecisiete de julio de dos mil trece

interinstitucional de apoyo a las familias dos mil once dos mil quince ese documento lo denominaron estrategia vasca para las familias no me lo invento esto está escrito

el gobierno consideraba necesario priorizar ámbitos de actuación y acciones estratégicas adaptándolo a las nuevas necesidades que se van detectando en el observatorio vasco de familias estamos de acuerdo los ámbitos que impulsa esta reformulación son la conciliación de la vida familiar personal y laboral la parentabilidad positiva la solidaridad intergeneracional y las ayudas económicas que se van a destinar a este fin y desde luego hemos visto varios debates en este parlamento donde hemos hablado de las ayudas a las familias de las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar y también hemos

los socialistas solicitamos ese documento al gobierno y asimismo también las actas de las reuniones del consejo vasco de familia

dos porque la tercera no tenemos aún comprobamos que el gobierno se limita única y exclusivamente a dar datos de las ayudas económicas destinadas a las familias y las personas que se han

y que las familias son de rentas medias altas he de decir

más baja y me refiero a todo el mundo una realidad que no es nueva que se atenuó con la llegada de inmigrantes en la última década que ha sido frenada precisamente por la introducción de esta larga llamada crisis económica

supera al de nacimientos y los datos facilitados por el eustat señalan que la comunidad autónoma vasca está registrando un descenso en el número de nacimientos en torno a un siete por ciento lo que nos sitúa en registros del dos mil tres y desde luego esto es bastante preocupante

en la fecundidad de las mujeres y en la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral lo que lleva a retrasar la edad de maternidad

el departamento de empleo y políticas sociales modificó los decretos que regulan las ayudas económicas a las familias sin embargo existen también

entre expertos en concluir que las políticas públicas para favorecer la natalidad no pasan tanto por incentivos de carácter económico sino más bien por otro tipo de medidas que favorezcan la conciliación que fomenten la corresponsabilidad en el cuidado entre

y mujeres y que compartan la discriminación laboral de las mujeres que desean ejercer la maternidad

y del fomento de la natalidad volvimos a preguntar al gobierno en noviembre del dos mil catorce

en este sentido y el gobierno nos dijo que estaba haciendo una profunda reflexión sobre el efecto que producen a la sociedad vasca el conjunto de políticas de apoyo a las familias que se están aplicando desde las distintas instituciones y que en el proyecto de presupuestos del dos mil quince estaba consignada una partida presupuestaria de treinta mil euros

y del fomento a la natalidad que estaría culminada a finales del dos mil quince me vuelvo a referir a este documento que

donde ya dice políticas de apoyo a las familias de euskadi análisis y propuestas y aquí ya

la respuesta manifestaba una indolencia impropia de un gobierno responsable

euskadi no contaría con una política operativa en esta materia hasta la próxima legislatura en opinión del grupo socialista el retraso es del todo injustificado y revela la desgana y la falta de iniciativa e ideas de este gobierno ante una cuestión a la que

con mucho interés una actitud que llevamos evidenciando durante toda las legislatura por eso

al gobierno si les parecía razonable que tuviéramos que esperar hasta el dos mil dieciséis para disponer de una política de apoyo a las familias y del fomento de la natalidad

y la respuesta fue qué hora es manzanas traigo porque el gobierno volvió a contestar que estaban

reflexión y que llevan haciendo durante toda la legislatura además estaban haciendo un análisis comparado con las políticas que se están llevando a cabo en la unión europea que se supone que este parlamento desconoce y no es cierto porque está en el informe extraordinario del ararteko

a la que está tardando tanto en llegar

que es el gobierno de las personas y de las familias y ese análisis comparativo con las políticas de la unión europea en fin nosotros

organizadas por el departamento de empleo y políticas sociales sobre la paternidad positiva donde anuncian un plan de inversión en la infancia y la familia que yo señora garrido igual sus cifras y las mías

pone que son ochocientos millónes hasta el dos mil veinte dividido entre cuatro serían a doscientos millónes por año

no le he entendido bien de cualquier manera vuelvo a decir que

anuncio a mí me gustaría que este gobierno me contara qué ha hecho por nosotras las familias por nosotras las personas en qué nos está apoyando porque evidentemente en las ayudas económicas puede ser un incentivo pero también han llegado tarde hemos debatido sobre esta cuestión no obstante nosotros

hasta la fecha al contrario estamos poniendo en valor algunas cuestiones pero es verdad que la situación ha cambiado y preocupantemente porque yo quiero

hacia una estratégica vasca de inversión en la familia y en las familias diagnóstico base teorías objetivos y propuestas

la estrategia que anuncia el gobierno pues bueno aquí recoge una serie de ideas pero

simplemente son unas ideas que me parece muy interesantes que

cambios porque ha aumentado la pobreza infantil y la desigualdad porque las dificultades para la emancipación juvenil son cada vez mayores y por esto están pidiendo crear nuevas familias porque hay una desigualdad de género

y unas dificultades para conciliar la vida laboral y familiar

radica en la igualdad de género y eso lo debemos de tener muy presente en la igualdad de género y en la corresponsabilidad porque hay un déficit vasco en relación a las políticas familiares es la política que menos desarrollada está en euskadi pero esto es la profunda

son bastante acuciadas y que las previsiones demográficas es que para el dos mil veintiséis disminuya el treinta por ciento de los nacimientos esto unido al incremento

en el envejecimiento creo que tenemos señores un serio problema estructural y esto requiere más que de un plan eskerrik asko

estos últimos años se ha realizado un esfuerzo evidente pero a su vez debe reconocerse que las políticas de apoyo a las familias en nuestra comunidad

no es ajena sino que forma parte de las políticas sociales del gobierno y por eso porque evidentemente existe mucho trabajo por hacer todavía en este ámbito el gobierno vasco viene trabajando en la elaboración de una estrategia de apoyo a la familia y la infancia

y fundamental a nuestro juicio hemos de abandonar la idea de centrar

de los cuidados hemos de avanzar la estrategia debe suponer un gran pacto de país

de todos los niveles institucionales de euskadi así como de los distintos agentes sociales y grupos políticos

familia estrategia orokorraren diseinuan por lo tanto queda meridianamente clara la importancia que este gobierno le da

y su firme voluntad de continuar avanzando para mejorar la situación de las mismas entendemos

como el núcleo básico de nuestra sociedad por eso

parte de la idea de que el gasto aparejado a las políticas de apoyo a la familia es una inversión en el futuro y se debe afrontar con la perspectiva del medio y largo plazo

y también el del grupo nacionalistas vascos es reforzar las políticas sociales y enfocarlas a la familia esencial de la convivencia la estrategia es una hoja de ruta que contiene un decálogo de propuestas para crear un marco general propicio para el desarrollo de las personas muchas de las medidas deberán ser debatidas y consensuadas con instituciones y agentes sociales que consisten

y necesidades de servicios hoja de ruta que deberá ser discutida y consensuada con el resto de instituciones a gentes y grupos políticos

la estrategia parte del derecho de todas las familias con hijos e hijas

recursos económicos mínimos ni a los equipamientos y actividades socioculturales

que estarán abiertos a toda la población infantil y juvenil de euskadi y especialmente a las personas con mayores dificultades socioeconómicas la estrategia insisto contiene un decálogo de medidas concretas para seguir avanzado en la protección de la familia y la infancia que ya tendremos tiempo de debatir